gracias presidenta buenos días a todas y a todos

isasi jauna eta hori da ni harritzen nauena lo que yo quiero decir señor isasi es que no solo se ha hecho

si no que los diferentes gobiernos durante años se han pasado de frenada y esta es la realidad de los hechos arazoa ez da gutxi egin dela baizik eta nola egin den

presioa eta gehiegikeriak en nuestra opinión por lo tanto se ha hecho un esfuerzo extraordinario durante los últimos años para impulsar

se han pasado de frenada y han aplicado políticas lingüísticas que han llevado a cabo y han producido abusos

e imposiciones y han sido vulnerados muchos derechos ciudadanos como consecuencia de estas políticas aplicadas durante largos años y es lo que nosotros hemos querido denunciar

cualquier cosa que se haga les parece poco pero qué más se puede hacer

a la sociedad y a nosotros esto nos parece ciertamente grave cuántos recursos públicos hemos destinado

durante estos treinta años cuánto dinero público se ha destinado cuál es el esfuerzo extraordinario que hemos hecho los ciudadanos vascos con nuestros impuestos para destinar grandes cantidades de recursos públicos

esa cuantía posiblemente sea incontable se ha hecho por lo tanto un esfuerzo extraordinario hemos dedicado

y viene usted aquí a decirnos algo así como que prácticamente no se ha hecho demasiado o que se pueden hacer muchas cosas porque hay determinados derechos lingüísticos que han sido vulnerados no estamos por lo tanto en absoluto de acuerdo para acceder al empleo público se han exigido conocimientos lingüísticos en euskara claramente excesivos y abusivos se ha exigido

a muchos empleados públicos que en absoluto lo necesitaban para realizar perfectamente su trabajo y se han cometido abusos se han producido discriminaciones ha habido imposición y esto es lo que nosotros queremos denunciar con esta enmienda de totalidad que hemos presentado

y en muchos casos la imposibilidad evidente para que las familias puedan libremente matricular a sus hijos en el modelo a

absolutamente imposible ha sido que determinadas familias libremente puedan matricular en el modelo a esta es la realidad de los hechos y resulta que usted viene aquí a plantear al gobierno que ponga en marcha un plan específico otro más pero cuántos planes existen ya y cuántos han puesto en marcha durante estos años para impulsar

el uso del euskera y usted nos plantea un plan específico nuevo para proteger los derechos lingüísticos de los vascoparlantes en un ejercicio

absolutamente inaceptable y vuelven a plantear nuevas medidas aunque sin especificar exactamente cuáles

vulnerados eche la vista atrás observe la situación del euskera hace treinta años y la situación del euskera ahora analice el uso del euskera que se hacía entonces y el que se hace ahora qué más quiere usted que se haga

cuántos abusos más cuántas discriminaciones más lo curioso es que ustedes reivindican a menudo

derechos que no existen el derecho a la autodeterminación

a uno le respondan en el idioma que quiera derechos que no existen mientras que derechos que sí existen

y otra cosa una cosa es que los ciudadanos tengan derecho a utilizar el euskera y otra cosa muy distinta señor isasi es que todos tengan que aprenderlo y utilizarlo es cosa muy distinta y creo que ustedes no son capaces de distinguir una cosa de la otra una cosa es que las personas tengamos el derecho a utilizar el euskera obviamente y otra cosa es pretender imponer una especie de nuevo derecho según el cual

a obligar a utilizar el euskera también a aquellas personas con las que hablan o a las que se dirigen especialmente en el ámbito privado empresarial o en el ámbito del comercio y de ahí nuestra enmienda de totalidad en la que proponemos a instar al gobierno vasco

imposiciones abusos y discriminación lingüísticas y por eso exigimos al gobierno seguramente en vano

para expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de euskadi y por eso instamos al gobierno como siempre lo hemos hecho a impulsar y defender una política lingüística exenta de abusos discriminaciones e imposiciones a defender el bilingüismo voluntario

y a tener siempre presente que las lenguas no tienen derechos y que los derechos por lo tanto obviamente son de los ciudadanos

voy a leer brevemente alguna cosa que altuna en un articulo reciente planteaba y escribía y creo que es ciertamente interesante decía

pero el hecho de tener que articular una ley para proclamarlo nos da cuenta del grave deterioro que había padecido su uso y su estatus cultural

aquella ley suscrita por la casi totalidad de las formaciones políticas vascas está en el origen del enorme

y añade pero el euskera además de ser un útil de comunicación se ha utilizado en nuestros días como marcador ideológico por parte del nacionalismo

estos usos espurios han grabado al euskera negativamente y es posible que hayan contribuido a su desprestigio y desuso y añadía y termino muchos conocen el euskera pero solo algunos lo usan como vehículo usual de comunicación el euskera el peaje para lograr prebendas y privilegios pero alcanzados estos el euskera ha declinado como lengua de uso estoy de acuerdo con estas palabras

altuna y obviamente votaremos en contra de la transaccional que ustedes han firmado porque queremos cambiar la normativa injusta

y votaremos por lo tanto nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

muchas gracias señora presidenta señorías el estatuto

a todos los ciudadanos el derecho a conocer

tres años después cuando la ley del euskera reconoció una serie de derechos lingüísticos concretos en el ámbito de la administración en el de la educación

y la obligación para los poderes públicos de tomar medidas que garantizasen esos derechos y son como hemos defendido aquí siempre somos los ciudadanos los sujetos de los derechos

por ello la vulneración de esos derechos cuando se produce efectivamente supone

una discriminación y debemos rechazar cualquier tipo de discriminación por motivos de lengua nosotros muchas veces venimos aquí a hacerlo a rechazar cualquier tipo de discriminación por motivos lingüísticos pero de qué vulneraciones estamos hablando hoy

porque usted luego trae los estudios de no sé quién del otro de un amigo suyo de no sé qué historias que se inventan ustedes que tienen muchos observatorios varios

y dice que en dos mil doce se han producido

trescientos veinticinco incidencias y vamos a desgranar cuáles son las incidencias de elebide ciento sesenta y seis por la web ciento treinta y nueve e mails correos electrónicos que han llegado con algunas quejas ciento sesenta y seis por la

eso es todas las incidencias de dos mil doce de las cuales

y aportaciones consultas que se han hecho de las cuales sesenta y dos las vamos a apartar porque responden al ámbito privado que es que he entrado en una tienda y no me han atendido en euskera que si

y nos vamos a que solo son quejas con respecto a las administraciones públicas medios de comunicación

doscientos treinta y seis de las cuales setenta y ocho son quejas

señor isasi estamos hablando de que setenta y ocho son quejas porque hay señales de tráfico que no son bilingües porque hay

solo las han visto en castellano o rotulación de algunas obras se refieren a eso

lo explica en su memoria solo setenta y seis quejas en dos mil doce se refieren a quejas por no ser atendidos en euskera

después de todos estos casos dramáticos que usted nos ha contado aquí esta mañana resulta que en el año dos mil doce en toda la comunidad autónoma vasca solo setenta y seis quejas

algunos los mismos que se quejas varias veces no lo especifica elebide

en euskera por las administraciones públicas bien

otras ochenta entre ochenta y cien son porque han recibido algún escrito de la administración en el que no es que no sea en bilingüe sino que el euskera aparece de una manera subordinada en menor medida que el castellano etcétera por parte de algunas administraciones que están haciendo el esfuerzo por introducir en euskera en sus comunicaciones pero

que no está el euskera en la misma proporción en algunas administraciones en su comunicación escrita o en su publicidad

esas son las quejas y no otras aquí hemos escuchado algunas veces cómo casos dramáticos de que llegó una niña

comienzan a aparecer estos casos

en osakidetza han aparecido solo veintiuno quejas en dos mil doce referidas a osakidetza

que han traumatizado a los niños porque el pediatra no sabía euskara porque resulta que no le han operado a alguien porque no le sabían entender la enfermedad que tenían no

porque no se les ha atendido por teléfono en euskara cuando han llamado para pedir cita

yo porque la papelería en hospitales recintos médicos en algunos casos solo estaba en castellano la papelería y porque la rotulación en algunos de los edificios no estaba en euskara bien estos son los tres casos

entonces hay gente que oye ha considerado que se vulneraban gravemente sus derechos

pendiente con una estructura y una serie de personas pendientes de recibir estas quejas que hay una falta de ortografía en algunos carteles de los hospitales etcétera bien estas son las quejas que recoge la memoria de elebide

usted conoce la memoria igual que yo elebide se refiere a estas

las quejas y las incidencias que recoge elebide con lo cual

esto me parece que es una tomadura de pelo señor isasi una tomadura de pelo que usted venga aquí a decir

vulneración grave de sus derechos yo claro en este país ya se ha hablado tantas veces de vulneración de derechos que claro

las palabras se retuercen y se puede hablar aquí de vulneración de derechos para cualquier cosa ahora

quejas de ciudadanos que se quejan en elebide porque

relacionarse en castellano con algunas administraciones empiezan a aparecer usted lo conoce en la memoria aparece y eso que todavía en el país vasco no sabemos que los castellanohablantes nos podemos quejar la gente no lo sabe

y reclamar nuestros derechos y algunos sabe usted lo que pasa que lo saben pero tienen miedo a hacerlo sí no se atreven a hacerlo no vaya a ser que te consideren antivasco o mal vasco o te señalen en zarautz

se comunique contigo en castellano y se enteren tus vecinos pero ya empiezan a aparecer en elebide

que en poco tiempo seguramente igual va a haber más quejas de vulneraciones de derechos en castellano se lo pronostico igual para entonces

este instituto que recoge tantas vulneraciones de derechos humanos yo creo que

las denuncias que diariamente podríamos hacer y traer aquí igual ocupamos todos los plenos de la cámara solo del lenguaje utilizado de la vulneración de los derechos por parte de e i te be en su rotulación

qué podemos decir de los medios de comunicación públicos en el país vasco su paisaje infográfico su rotulación solo en euskara creen que vitoria se traduce en euskara en gasteiz

no saben que vitoria es vitoria gasteiz su nombre oficial que pamplona es pamplona y que en e te be uno

y que los nombres después los cambian pero bueno no había pensado que esto

porque yo pensaba que hay derechos fundamentales y otros que no lo son y en este país se han vulnerado muchos derechos por razones de lengua sí se ha limitado el derecho a estudiar en la lengua materna que es un derecho fundamental reconocido

limitar el derecho a estudiar en lengua materna es un derecho fundamental reconocido en todo el mundo civilizado

limitar el derecho al trabajo por razones lingüísticas es un derecho fundamental que se vulnera ha habido vulneración de derechos fundamentales por razones lingüísticas en este pais

de los ejemplos que ha puesto usted nada que se le parezca ni de lejos

muchísimas personas miles de personas viendo limitados sus derechos fundamentales

enorme para que usted le atiendan por teléfono en euskera cuando llama a una administración pública

en euskera esta sociedad ha hecho un esfuerzo enorme

conocido suyo a esa persona que cuando llama al servicio de atención a domicilio le puedan atender en euskera y ahora todavía tiene que esperar porque igual las personas que le podían atender estaban trabajando como le dijeron esta sociedad ha hecho un esfuerzo enorme como le han dicho antes un esfuerzo económico enorme y un esfuerzo personal enorme

a quejarse cuando esta sociedad lleva haciendo un esfuerzo enorme para tratar de que todo el mundo pueda convivir aquí de manera razonable y para que no se puedan utilizar las lenguas como un

y después de que usted conoce todo el sufrimiento que ha habido tanta gente sufrimiento de verdad

no aporta nada usted al consenso solo busca acusaciones contra los esfuerzos de normalización del euskera cuando el castellano está en una situación

ponga usted en todo su discurso donde ha puesto euskera ponga castellano a ver que es lo que pasa y

vulnerar en un solo caso el derecho a ser atendido en euskera

paliarlo cualquier vulneración de un derecho nos tiene que ocupar y nos tiene que preocupar la vulneración no

ha hecho del asunto que nos trae aquí no es motivo

señor isasi nosotros lo que le queremos decir es que

los derechos que se vulneran fundamentalmente los que se han vulnerado durante los últimos tiempos son precisamente los derechos de los ciudadanos que sufren esa amplia normativa que nosotros queremos derogar o modificar son

los ciudadanos que han sufrido los usos y las costumbres de los distintos gobiernos durante los últimos años para imponer del euskera esa gran obsesión de intentar imponer no solamente el aprendizaje o el conocimiento sino el propio uso del euskera al conjunto de la sociedad y como consecuencia de esa obsesión que usted y ustedes y aquellos y algunos de aquellos y otros que no están aquí ha habido muchos ciudadanos que han sufrido graves injusticias que ustedes

se han producido el problema es que da la sensación de que ustedes únicamente se relacionan con los suyos relaciónense también con los que piensan distinto a ustedes entonces comprobarán que efectivamente durante los últimos años ha habido gente que ha tenido

porque se ha sentido claramente perjudicada y discriminada porque se le ha intentado imponer el uso del euskera

es así es un hecho objetivo ha habido graves injusticias durante los últimos años como consecuencia de una política lingüística

y no digamos ya en los últimos tiempos por parte de la diputación foral de gipuzkoa he hablado del acceso al empleo público de las excesivas exigencias de conocimiento lingüístico en euskera para poder acceder a un puesto de trabajo público he hablado de las trabas que han existido y que siguen existiendo para que las familias puedan matricular a sus hijos en el modelo a

a sus hijos para que puedan estudiar en castellano ha existido por no hablar de los recursos públicos que hemos destinado miles de millónes de euros durante décadas para fomentar y

pero lo que no se puede hacer es imponer al conjunto de la sociedad

ni siquiera el gobierno anterior socialista quiso cambiarlo

todos los gobiernos durante todos los años de la democracia se han pasado de frenada porque han optado por la imposición y por la gran

representan el talibanismo lingüístico de toda la vida yo en todo caso

señor portavoz del grupo eh bildu hablaba usted de lasaitasuna de verdad

relájese no intenten imponer el euskera al conjunto de la sociedad relájense hablaban de

de igualdad entre lenguas pero es que permanentemente olvidan la situación del euskera de hace treinta años

es lengua oficial porque todos los ciudadanos la conocen mientras que el euskera es lengua oficial y se decidió en su momento que el euskera fuera lengua oficial

el uso del euskera y obviamente esto es importante pero esto no puede significar ni tiene por qué significar la conversión lingüística de toda la sociedad

que hablaban euskera sin embargo se decidió que el euskera fuera lengua oficial para fortalecer el uso del euskera pero esto no puede significar como consecuencia de que sea lengua

y mucho menos la conversión forzosa de toda la sociedad que es lo que usted y ustedes y aquellos de allí

no vale todo para fortalecer el aprendizaje y el uso del euskera

que es lo que nosotros defendemos con nuestra enmienda la libertad para que cada cual decide libremente si quiere aprender el euskera si quiere utilizarlo relájense por lo tanto

no se obsesionen con tratar de imponerlo otra vez

al conjunto de la sociedad que es lo que se ha hecho en los últimos tiempos obviamente otra vez la llamada el consenso obviamente que implica que nada cambie y tapar las injusticias el consenso que implica silenciar y callar al que piensa distinto el consenso que pretende impedir el debate pues habrá debate en el futuro

por cierto pero si se plantean nuevas medidas para seguir imponiendo el uso del euskera

no con intención de ningún consenso cuando además es imposible sino sobre todo para denunciar discriminaciones abusos y enormes injusticias que se han venido produciendo consenso en todo caso el suyo para que todo siga igual para tapar las injusticias y para silenciar

señor isasi yo creo que por mucho que se dramatice la demagogia sigue siendo demagogia yo creo que lo que ya hecho usted aquí es una dramatización haciendo una demagogia que no se corresponde

con el asunto grave realmente que se suscita de este debate lingüístico

dice usted que no conocer el euskera supone un déficit y yo se lo reconozco tengo este y otros muchos

para tratar de imponer a los demás porque nos considera con defecto que ya venimos con defecto de fábrica

las políticas de imposición son perversas en materia lingüística ustedes están haciendo un daño terrible al euskera no están sabiendo aprovechar el enorme esfuerzo que está haciendo esta sociedad en favor del euskera

en ninguna otra sociedad del mundo se ha hecho un esfuerzo tan enorme normativo legislativo económico en ninguna del mundo dígame usted dónde

hace años a la comisión de educación nos llevaban por ahí de excursión

poco nos caímos al mar estábamos buscando una ikastola allí en gales y buscando una ikastola por poco nos caemos al mar no había casi ni una ikastola galesa y nos

qué se hace por ahí en política lingüística en ninguna parte del mundo

nunca y ustedes lo están desaprovechando lo están tirando por la borda porque el uso no aumenta claro el uso no aumenta y cómo quieren que aumente el uso poniéndonos una escopeta

porque el uso nace de la libre adhesión de la libertad de las personas no de la imposición eso es lo que ustedes no comprenden y están desaprovechando mucho esfuerzo de esta sociedad

me habla de la tradición liberal y yo desde luego claro que la reivindico y por eso le digo estas cosas porque no tengo ningún complejo

generaciones y siglos hablándolo desde luego que sí no tengo ningún complejo y por supuesto que reivindico

tradición liberal y foral vasca esos liberales fueristas que son los que defendieron el euskera

no como hacen ustedes que lo usan para dividirnos para separarnos yo reivindico aquí el espíritu liberal fuerista vasco que es el que mantuvo vivo el euskera

no como un arma arrojadiza entre vascos para dividirnos para separarnos

eso es inaceptable y ese es el daño que están ustedes produciendo a la lengua

a mí y voy a terminar en esto hay algo que me da tristeza y que es que el partido socialista venga aquí y firme por mucho que el papel lo aguante todo y que al final no dice nada lo que han firmado

a firmar con estos nada en materia lingüística

con estos sí con estos que han hecho tanto daño al euskara

a firmar como han hecho tantas veces firmando y tragando que la mitad de los problemas lingüísticos que tenemos en euskadi es

y siento mucho y lo digo con dolor de corazón que han tenido la oportunidad de gobernar y no se han atrevido a cambiar casi nada y lo poco que han cambiado es porque nosotros hemos metido una presión

y usted se cree que se lo agradecen ustedes seguirán siendo como hasta ahora después de haber hecho con ellos

y por mucho que ahora firmen con ellos pasado mañana cuando ustedes tengan responsabilidades vivirán lo mismo porque a ustedes les desprecian les rechazan y su complejo

maneiro jauna si no te dejan respirar

entonces si a mí me dejan respirar naturalmente pues no me obsesiono lógicamente

yo creo que lo entendemos todos y si todos los gobiernos según usted se han pasado de frenada en este tema de la recuperación del euskera a lo mejor

igual puede verlo desde ese punto de vista no bueno la lengua preeminente se puede ver amenazada al ver que la otra lengua se está equiparando

lo vive usted con mucha agonía el querer respetar los derechos lingüísticos del euskera no quiere decir que queramos vulnerar los derechos lingüísticos de los castellano parlantes

con que lo estamos haciendo con amplios consensos y eso me parece que se ha visto y oyarzabal jauna el uso nace de la libre accesión es verdad tiene usted razón

ese uso y es que si una persona vasco parlante hace

una respuesta natural para ser reconocida su decisión y poder llevarla naturalmente

en que la iniciativa de los de eh bildu era bastante naif verdaderamente porque

a traer un debate que realmente lo traía llevado por los pelos fruto de un estudio o del resumen del trabajo de elebide pero realmente nosotros cuando trabajamos en favor del euskera lo hacemos desde el convencimiento

y el euskera y que todos los ciudadanos tienen derecho a comunicarse

en las dos lenguas y nosotros trabajamos buscando el máximo consenso para que eso sea posible y lo garantizamos por lo tanto complejos ninguno convencimiento cosa que igual otros no tienen porque no lo tuvieron en su momento cuando se hizo el estatuto de autonomía y no lo han tenido en otros momentos

que viene de un partido sin ideología es una ideología hecha de retales en función de la conveniencia del momento y de las olas sociales fácil bien

al estado no creen ustedes en el estado de derecho solo cuando este les conviene cuando las sentencias son favorables estupendo cuando no son favorables a sus supuestas ideas se mantienen en contra por lo tanto son iguales que estos e iguales que estos

se tocan desde luego nosotros creemos que el euskera es una lengua que hay que cumplir la normativa y facilitar su conocimiento y hay que protegerla

está en minoría y es una lengua minoritaria por eso también es por lo que hemos firmado esta iniciativa que por cierto la verdad es que lo que viene a decir de lo que decía este señor que realmente era aparte de naif era un poco saliéndose del tiesto es que se siga cumpliendo las leyes vigentes

firmada por los tres grupos la verdad tendrán que ser ustedes quienes lo expliquen y nosotros los socialistas seguiremos defendiendo el euskera

egitea lanpostuen alde egitea como señalaba estamos en un momento muy importante de este tema un tema que no es nuevo que ha venido o que entró a este parlamento hace bastantes meses

a nuestro grupo parlamentario lo que le mueve es concitar la unanimidad la misma unanimidad con la que entró a este parlamento esa ha sido la intención con la que hemos trabajado este tema con la que hemos trabajado este tema con los trabajadores de holtza y desde luego esa es la intención que vamos a trasladar hoy

dado que hay una enmienda de transacción acordada por la mayoría de los grupos de esta cámara y espero que secundada por la unanimidad de los grupos de esta cámara es una iniciativa que pretende dar continuidad y sentido a lo que en su día ya hicimos en este mismo parlamento que era mostrar una solidaridad activa con los trabajadores

y desde luego una apuesta y un compromiso con sus empeños por seguir manteniendo sus puestos de trabajo y la viabilidad de una empresa que puede y debe ser también estratégica aunque por su dimensión ocupe menos titulares que otras

porque esa enmienda también señalaba la necesidad de la viabilidad del sector porque no hay datos que demuestren que ese sector sea inviable

de manera bastante infame mientras que no podían hacer cargo a la carga de trabajo que todavía en ese momento en el momento del cierre tenían y desde luego también se señalaba en esa

la necesidad de que se incluyera a esta empresa dentro de las empresas llamadas estratégicas para este gobierno o de aquellas empresas

de nuestro país ese era el arranque del debate que concitó la unanimidad de los grupos esa es la lógica que hemos mantenido en todo este tema como señalo en contacto directo con los trabajadores y además entendemos

por sus rifi rafes dialécticos y por sus confrontaciones políticas pocas veces ideológicas políticas siempre

que aprueba o a las declaraciones que señala y creemos

hace precisamente eso darle un valor al parlamento en la medida que le otorga un seguimiento una acción a una declaración creemos que la

con la que hemos alcanzado el acuerdo permite que el futuro

es decir la solvencia económica la necesidad de adecuar las instalaciones para

en la recuperación progresiva de los puestos de trabajo de los trabajadores afectados

y en una internacionalización de la actividad que ya venía dándose antes del cierre y que desde luego se podría potenciar más pero no se puede potenciar de cualquier manera y por eso metemos

que el gobierno vasco eleve un informe al juzgado de lo mercantil de vitoria gasteiz porque es necesario que ese juzgado sepa cuál es la posición y cuál es la valoración que el gobierno vasco hace sobre las diferentes ofertas que hay encima de la mesa porque como ya señalábamos en la interpelación no todas las ofertas dicen lo mismo no todas las ofertas si quiera

y porque además no todas las empresas cumplen con esos criterios que la propia consejera señaló como criterios necesarios

el sector de transformación de la madera puede tener algún grado de desarrollo a futuro por tanto por lo que queremos que esta iniciativa

en el juzgado con un informe dado que en su día aportó fondos

aunque no sea una actitud y la hemos criticado en otras ocasiones recurrente la del gobierno la de personarse ante empresas en quiebra o ante procesos de cierre concursal creemos que es bueno

en lo que tiene que ver con la destrucción de empleo se replantee esa posibilidad el gobierno siquiera aunque sea en este caso

seguir debatiendo y discutiendo en este parlamento en todos aquellos procesos o concursos en los que el gobierno pueda tener algo que decir pero además creemos que es importante porque si no se eleva ese informe el administrador judicial puede elevar

ha sentenciado o ha decidido como necesario y como imprescindible para garantizar la viabilidad del sector y para garantizar la recuperación de puestos de trabajo porque ya señalábamos en la interpelación que a lo largo de todo este proceso hemos asistido a muchos hechos curiosos pero al menos a dos que a mí me gustaría referir y voy finalizando

asistir a la presentación de una oferta hasta el día de hoy opaca escudada en la presentación de un abogado que no ha tenido la deferencia de reunirse con los trabajadores pese a que los trabajadores de manera insistente han solicitado esas reuniones para poder conocer cuál es el proyecto

coincidía con lo que este parlamento señalaba que era no solo la solidaridad

sino su apoyo a la lucha que estaban emprendiendo por recuperar sus puestos de trabajo y en segundo lugar porque en algunas de las ofertas justo en la misma que acabo de señalar el plan de viabilidad que se detalla es un plan de viabilidad que se utilizó hace año y medio para intentar

que un plan de viabilidad presentado hace año y medio para renegociar una deuda no parece el mejor plan de viabilidad y desarrollo industrial para una empresa y que en todo caso lo que puede evidenciar es la falta

de esa oferta y sí la voluntad por hacerse con los activos de la empresa en cualquier caso creemos que el informe que haga el gobierno vasco puede reequilibrar esa lectura que pudiera darse en función de esa nula atención a los trabajadores que se ha tenido por parte

y desde luego nos parece que es del todo de recibo hacerlo porque además el contexto ha cambiado porque ya no

está disminuyendo sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción inmobiliaria y que por tanto la diversificación en la transformación de segunda y tercera generación

pero en cualquier caso finalizo ya son días decisivos como señalábamos en la interpelación son estos días y no es una forma retórica de hablar sino que es a la realidad es en estos días en esta quincena cuando se puede estar discutiendo qué futuro le depara a lo que era holtza y sobre todo qué futuro y es lo que más nos interesa

y desde hace meses se encuentran en desempleo porque en todo este tiempo y cada día que no se toma una decisión las cosas van empeorando y porque no es menos cierto por desgracia ya se han deteriorado cosas producto del abandono y dejación al que las instalaciones ha estado sometido mientras se mantenía todo este proceso deliberativo en los juzgados es por tanto por lo que pedimos

no solo la implicación del gobierno vasco sino también reconocer aquello

de ajustarse a lo que fue una decisión parlamentaria que no era otra que la de defender la viabilidad del sector y la defensa de los puestos de trabajo

cuál ha sido el procedimiento las diversas iniciativas que hemos tenido en esta cámara sobre la empresa holtza y la interpelación que

se sustanció también en esta cámara desde el grupo popular queremos resaltar el trabajo la constancia y la corrección de la parte social los trabajadores

en otros foros y en esta propia cámara todo ello con el ánimo de buscar un inversor que pueda reactivar la empresa y volver a ser líderes en el sector de la madera

felicitarles porque no es habitual un comportamiento similar de la parte social nuestro grupo presentó una enmienda a la moción presentada por eh bildu porque entendíamos que la moción no reflejaba de manera clara lo que en estos momentos es necesario

y lo que realmente se necesita y es lo que en este momento se está valorando son los planes de viabilidad presentados por los potenciales inversores para hacerse con los activos de la empresa holtza y en estos términos

sobre la viabilidad de las ofertas presentadas para la adquisición de la concursada holtza y lo remita al juzgado de lo mercantil como este matiz

de la enmienda de transacción desde el gobierno vasco la diputación foral de álava la parte social y esta cámara coincidimos en el objetivo para comenzar una nueva etapa en holtza buscar un inversor sólido potente conocedor del sector que vea oportunidades de futuro a esta inversión

los materiales los trabajadores su experiencia así como la situación estratégica

boca arriba que muestre verdadero interés por explorar estudiar y desarrollar todas las opciones reales que ofrece la empresa para comenzar una nueva etapa y volver a ser líderes en el sector si esto se consigue sería un éxito principalmente para la parte social los trabajadores a los que reitero

por su constancia y tenacidad eskerri asko

en cuanto a las ayudas que existen en vigor como por el otro lado los criterios reseñados a la administración concursal esto fue exactamente lo que la propia consejera nos dijo

en el pleno lo que se ha reseñado desde el gobierno la administración concursal y al juez ha sido que el gobierno vasco y en este caso la diputación de álava también espera

que incorporara los siguientes aspectos como mínimo una solvencia económica financiera de los promotores garantizada un posicionamiento de esos promotores en el mercado una capacidad de gestión como empresa de tercera transformación el desarrollo de nuevos productos e inversiones garantizando además que esto sea

de internacionalización cómo no que nos permita acudir con garantía después a poner a disposición de esta empresa

las nuevas ayudas que vaya a poner el gobierno ibilbide honetan bai eta

gracias presidenta buenos días señorías en realidad tenía previsto no bajar a la tribuna

pues no había mucho más que decir a parte de lugares comunes no obstante en atención a los trabajadores

haciendo un papel de un trabajo importante como ha destacado la señora mari carmen lópez de ocariz

que se juegan en estos momentos en los que el administrador

por razón de todo esto y teniendo en cuenta digamos el papel que han

que efectivamente hay que defender las mejores opciones en este y en otros casos para el futuro de las empresas que se encuentran en un mal momento decir por otra parte que

cada vez es más importante y así lo destacaba la propia consejera en un conocido foro donde la participación de los trabajadores en la gestión en la propiedad o incluso en los beneficios puede ser

donde los grandes acuerdos entre la parte social y económica le den mayor

por tanto nada más que decir congratularnos por el acuerdo alcanzado por el amplio consenso que esperamos que siga manteniendo la línea de unanimidad que se inició

votaremos a favor de la transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna

hoy volvemos a recuperar una iniciativa que hace ya más de dos décadas llegó por primera vez a este parlamento vasco y hay que reconocer que

aunque también es justo reconocer que el gobierno liderado por el lehendakari lópez avanzó en el propósito de desarrollar un pts de zonas canterables en el año mil novecientos noventa y dos año en el que por primera vez llegó

en una sesión plenaria se le recomendó al gobierno elaborar un plan territorial de minas

en ese mismo año el departamento del gobierno vasco elaboró un proyecto denominado plan de zonas canterables

de aquellas masas de caliza en la comunidad autónoma que se consideraron más interesantes

económico denominado proyecto de explotación subterránea de áridos calizos estimando costes y sobredimensionamiento

actualizando y ampliando en su caso los estudios desarrollados en años anteriores con esos antecedentes

estamos casi parecido que hace veintiuno años desde el año dos mil cinco de la mano de los socialistas vascos y como portavoz con idoia mendia en este parlamento ha estado sobre la mesa la necesidad de regular la explotación de áridos en euskadi

por los sectores implicados canteros con canteras por explotar y pocos derechos queriendo ceder instituciones a las que ya se les exigió un importante acuerdo institucional

afectados por las diferentes explotaciones en torno a sus lugares de residencia existen aún demasiados casos de flexibilidad en el cumplimiento de la normativa por parte de determinadas explotaciones que se convierten en intolerables cuando están situadas junto a parques naturales protegidos o incluso dentro de zonas declaradas protegidas

el gobierno debe establecer la estrategia territorial económica y medioambiental

las circunstancias han cambiado mucho y debiéramos acomodarnos a los nuevos tiempos también en este tema las necesidades de áridos hay que reconocer que son muy inferiores a las de hace unos años la oferta es suficiente para cubrir esa demanda y el flujo futuro de áridos dará respuesta al nuevo contesto

con unos objetivos claros el primero ordenar el sector desde los poderes públicos todos conocemos antecedentes sangrantes en este asunto

dar respuesta a políticas tan complejas como esta el segundo objetivo

a la hora de concurrir para obtener las concesiones de dichas explotaciones

para que no se actúe libremente sin tener en cuenta las consecuencias de las mismas y como tercer objetivo

y que han disfrutado de impunidad desde la administración no así desde los tribunales

gobernó durante algo más de tres años y este fue uno de los temas que estuvo en la agenda

los socialistas comenzamos con la protección legal que luego pasó por distintas vicisitudes judiciales y que posteriormente se avisó contaminada con otros debates ajenos entendimos la limitación legal como una tarea urgente para solventar el problema de agresión medioambiental

sentencias desoídas por los gobiernos anteriores y con las que el gobierno socialista eliminó la posibilidad de continuar con la explotación y por supuesto

por supuesto es justo reconocer no solo el trabajo de algunos partidos políticos sino el trabajo de algunos vecinos del pueblo de mañaria

con una iniciativa parlamentaria prohibimos de forma genérica la explotación de canteras y las sentencias en torno a este tema beneficiaron a quienes habían destrozado ese área del parque de urkiola durante la legislatura pasada y con el objetivo

el gobierno desarrolló un documento base a través del cual se actualizaban los estudios existentes

buscando una política de áridos dicho documento tenía en cuenta por un lado

por otro lado tratamiento de sobrantes de obra civil es decir reciclar los canteros se oponen a que ese árido se comercialice y por tanto nos encontramos con el contrasentido

sobrantes que solo puede utilizarse como relleno por último las canteras también están en contra de la importación de áridos

y que por ejemplo hay muchos países europeos como el caso de holanda y dinamarca

ante este escenario teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades el conocimiento que se tiene respecto al tema y los avances que se han dado en todo orden queda claro que es importante e imprescindible una política de áridos

de oferta y de demanda teniendo en cuenta la necesidad de actuar en este tema conociendo antecedentes sentencias judiciales los socialistas presentamos en su momento esta proposición no de ley hemos logrado un importante acuerdo a través de una enmienda transaccional

y en ese acuerdo se recoge la iniciativa original y las concreciones planteadas por eh bildu y que nosotros hemos considerado interesantes nos gustaría

creemos que no lo va a hacer porque no entenderíamos el cambio de posicionamiento en el año dos mil seis ante una proposición no de ley presentada por idoia mendia

tal como pedimos hoy el partido nacionalista vasco votó de forma favorable junto con el partido socialista ezker batua y eusko alkartasuna en ese debate

afirmó que tanto su grupo como el gobierno vasco en aquel momento liderado por el señor ibarretxe

consideraba el resultado beneficioso para la sociedad el paisaje y los recursos naturales el resultado de aquella votación fue sesenta y uno de sesenta y siete a favor el año dos mil diez ante una proposición de dani maeztu que solicitaba lo mismo que la iniciativa que debatimos hoy

y por supuesto el partido nacionalista votó a favor de la misma

de zonas canterables la enmienda presentada por el partido que sustenta el gobierno nos parece una declaración

porque no hemos visto en la última década por no ir más atrás que se haya hecho ningún esfuerzo por buscar consensos a los que ahora se apela a través de su texto por tanto esperamos una respuesta del portavoz del grupo nacionalistas vascos termino ya dando las gracias a los grupos

a votar favorablemente por las aportaciones dadas a través de esta enmienda a ver si hoy es el primer paso para que
después de veintiuno años existe un pts de canteras en euskadi nada más muchas gracias eskerrik asko

que a tenor de lo manifestado por la señora rojo más bien parece convertirse

a la problemática de las canteras en los espacios naturales y no es este el debate a nuestro juicio nos parece más coherente

preferimos manifestar claramente que en la actualidad no es necesario un plan territorial sectorial relativo a zonas canterables de nuestra comunidad

sino que queremos regularlas de otra manera queremos mantener una coherencia entre lo que décimos y hacemos

a pesar de que respecto a la problemática de fondo ya hemos hablado largo y tendido en esta cámara

breves referencias relativas a hechos y actuaciones que afectan de manera importante a la cuestión que hoy analizamos en primer lugar en el año mil novecientos noventa y siete fecha de aprobación de las directrices de ordenación del territorio

no se disponía de la información relativa a los posibles yacimientos mineros por eso se realizó una ordenación diferida

en la primera década del presente siglo se ha elaborado el inventario de las zonas con posibles aprovechamientos mineros ahora ya sabemos donde se hayan las zonas que contienen riquezas susceptibles de ser explotadas en segundo lugar

a las actividades mineras les acompañaba una imagen de un importante deterioro ambiental como se ha explicado aquí parcialmente entre los años dos mil seis y dos mil nueve se regula tanto la evaluación ambiental de su implantación como la gestión de los residuos que generan estas actividades y la recuperación de los espacios alterados se traspone a la normativa interna la pertinente directiva comunitaria y la resolución del problema de los residuos era una cuestión ampliamente demandada por nuestra sociedad ahora ya tenemos

en tercer lugar la regulación de estas actividades si quiera parcialmente se realiza en otros instrumentos de ordenación así por ejemplo

otro dato hace escasamente un mes hemos aprobado en esta cámara una ley

en la que se regula este tipo de actividades en los espacios naturales y no olvidemos que esta ley afecta al veinticinco por ciento del territorio de la comunidad autónoma finalmente recordar que en esta misma cámara la primavera pasada hemos aprobado una iniciativa mediante la que pedimos al gobierno que proceda a la revisión de las directrices de ordenación del territorio

supone replantearse todo el modelo territorial es volver al momento cero de la planificación es como situarnos en los años anteriores a mil novecientos noventa y siete obviamente entre las determinaciones a revisar se haya la relativa a la materia de canteras y no tiene mucho sentido que por un lado revisemos el modelo productivo de euskadi

se responde parcialmente a lo que preguntaba el señor maeztu de que hay que revisar el modelo productivo paro ya digo que no tiene mucho sentido revisar el modelo productivo y en paralelo por otro lado poner en marcha

por todas estas razones y hechos nuevos a los que nos hemos referido

político y social previo para encajar la regulación de las zonas canterables en la ordenación del territorio ya hemos dicho que no pretendemos que este tipo de actividades

en igualdad de condiciones que otras actividades y se analice su incidencia

de las áreas funcionales en que se dividen el país a los efectos

son herramientas adecuadas para resolver estos usos es más a nuestro juicio es aquí donde deben incorporarse deben ser

por tanto entendemos que es dar mayor fuerza política y mayor garantía jurídica al respeto

recogemos literalmente aquello que demandaban al final de la pasada legislatura los responsables de la materia aquello mismo que en esta misma tribuna demandaba reclamaba el señor unda en la época del gobierno del señor lópez el lehendakari lópez y queríamos retomar el asunto donde lo habían dejado los socialistas

a una especie de carrera estajanovista de ver quien presenta más iniciativas

aunque para ello hayan de renegar de los actos propios realizados en los últimos años

suscrita por el grupo socialista y por bildu con la que no estamos de acuerdo

y este es un plazo que no se puede cumplir y lo saben perfectamente los proponentes se solicita realizar en seis meses lo que se ha sido incapaz de hacer en cuatro años escasamente en este tiempo se podría contratar una asistencia técnica externa para realizar los trabajos que se demandan

gasto que nos ahorraríamos si se aceptase la enmienda propuesta por nuestro grupo se nos propone también que este pts tenga en cuenta el criterio de proteger el patrimonio cultural

algo que a nuestro juicio supone un desenfoque importante de la cuestión

es como reconocer que los valores culturales no pueden ser protegidos de otro modo lo cual obviamente no es cierto es como intentar regular

para pescar pero desde luego no es lo suyo porque no es lo suyo que un plan

estas deberán ser establecidas en las herramientas de planificación de protección cultural

por todas estas razones anteriormente expuestas nuestro grupo va a oponerse a la iniciativa

y vamos a mantener la enmienda presentada que recoge literalmente lo que el consejero socialista del ramo el señor unda solicitaba en esta misma cámara hace escasamente un año

de manera favorable la iniciativa original planteada por el grupo socialista vista la enmienda transaccional que han firmado y con quien han firmado esa enmienda transaccional y escuchados también a los diferentes portavoces que han intervenido finalmente upyd se abstendrá gracias

popular para fijar la posición de nuestro grupo respecto a la iniciativa que

referente a la necesidad de elaboración de un plan territorial sectorial de canteras para la comunidad autónoma vasca el grupo popular no presentó enmienda a

porque como ya manifestamos en enero de mil novecientos noventa y dos en marzo de dos mil seis y en marzo de dos mil diez nuestro grupo considera

de zonas canterables para la comunidad autónoma vasca y hoy vamos a votar a favor señorías más de veintiuno años solicitando este documento con amplias mayorías en esta cámara más de veintiuno años haciendo estudios y volviendo a rehacerlos más de veintiuno años sin ninguna

más de veintiuno años de incumplimientos por todos los gobiernos unos con mayorías absolutas bipartitos tripartitos nacionalistas o socialistas

que el grupo nacionalistas vascos manifiesta en esta cámara tónica de este periodo legislativo que parece que no era habitual

pedían en la anterior legislatura a pesar de que el lehendakari hace escasamente una semana manifestaba en esta

la coherencia como uno de los ejes fundamentales de su gobierno bueno ya empezamos con la descoordinación en cuanto a prioridades señor aldaiturriaga según sus argumentos ningún pts tiene sentido se los acaba de cargar todos tenemos los planes territoriales parciales y los pts

hemos perdido mucho tiempo y nos han engañado a todos porque era una figura que ustedes la han reivindicado aquí y le han dado la importancia que todos se la estamos dando señora rojo el gobierno

no hizo nada especial reactualizó los estudios que ya había nada especial y además

es conocida la incapacidad para avanzar más

eran incapaces de avanzar más y señorías portavoces que han intervenido se les ha olvidado justificar este incumplimiento porque ustedes han formado parte sus grupos

y algo deben de saber de esto coincidirán conmigo que aquí pasa algo raro que los que no hemos gobernado nunca

alcancemos a comprender y sería bueno que ustedes

para que sea incumplimiento tras incumplimiento

y la importancia de la elaboración da la impresión que da igual quien sea el lehendakari el consejero de industria o el viceconsejero

intocable ellos deciden me gustaría pensar que este gobierno además de estar tiene vocación de gobernar

entiendo señorías quiero decir que para el grupo popular es

empresarial de explotación de canteras pero que se debe de compatibilizar con el cuidado del patrimonio natural ecológico espacios protegidos etcétera y para ello es necesario establecer las medidas necesarias para minimizar el impacto que sobre el medio natural puedan provocar

es testigo de los abusos que en el tema de explotación de canteras se vienen produciendo en nuestra comunidad autónoma y por ello consideramos desde el grupo popular imprescindible y nos reiteramos en la necesidad de elaborar un plan territorial sectorial de canteras para
al comunidad autónoma vasca eskerrik asko

contestar únicamente al señor aldaiturriaga que comprendo que hoy usted tiene un papelón en el debate sobre el pts de canteras porque al final las palabras se las lleva el viento

recoge cada una de las iniciativas que sobre este tema ha hecho el partido nacionalista vasco y siempre ha votado de una forma diferente a lo que ustedes lo van a hacer hoy

se llama a eso hacer oposición cumplir el trabajo por el que estamos en esta cámara y sí que le pediría un respeto a los parlamentarios que presentamos una

y si no mire la hemeroteca de la legislatura pasada quién quería bloquear al gobierno con la presentación de iniciativas variopintas por definirlas de una forma educada intentando que el gobierno no diera a basto con la presentación de iniciativas

y siento decirle que seguiré así con cada uno de los incumplimientos que hace el pnv y con cada una de las preocupaciones que el partido socialista de euskadi tiene respecto al tema de medio ambiente

esta parlamentaria es portavoz le diré también que usted ha hablado del acuerdo institucional al que se refería el señor unda en la interpelación que hizo

digo yo que ya una vez de que el gobierno anterior

calizos del país vasco que era la previa para poder comenzar a

algo habremos avanzado digo yo de todas formas

con esto del cambio del modelo productivo y parece ser que todo ha cambiado tanto que necesitamos muchos menos áridos

hace justo un año que gobernaba el señor lópez pues le diré que bueno que puede hablar usted con la diputación que le compete al partido nacionalista vasco y que cambien los planes de gestión de las zonas protegidas porque las diputaciones pueden hacer mucho y el partido nacionalista tiene poder en una diputación

y que frena muchos otros cuando no les interesan los debates que se debaten en el parlamento vasco por otra parte le diré que usted dice que esta portavoz ha llevado todo a una preocupación o una obsesión por la cantera zalloventa pero es que lo que

con el partido nacionalista vasco gobernando en el país vasco era una barbaridad una atrocidad y una vergüenza

que ustedes tendrán que explicar por qué no se hacía yo no digo más que eso y entonces a partir de esa preocupación surgen muchas iniciativas como puede ser esta y usted no puede utilizar la modificación de ley de conservación de la naturaleza para meter también ahí

aquello era una modificación de ley concreta sobre un tema concreto y que se aprovechó para meter temas puntuales para proteger y poner medidas para proteger el medio ambiente pero esa modificación todo no lo cubre cuando la mayoría de los grupos parlamentarios de esta cámara entendemos

en fin quizás igual los equivocados seanustedes porque

en un año que no gobierna el partido socialista para que el partido nacionalista vasco haya cambiado de opinión ha reducido tanto la demanda de áridos tenemos una oferta

impresionante para dar respuesta a todo esto o qué es lo que ha ocurrido que qué ha ocurrido

otros estamos en la oposición y ustedes son así en función de la bancada en la que se sientan cambian de opinión y cambian de voto en las iniciativas que se llevan porque también habrá que decir señor aldaiturriaga que responsabilizar al partido socialista de euskadi de una política de treinta años me parece un tanto osado nosotros hemos gobernado en minoría tres años

siendo los responsables del departamento de industria con la dirección de minas dentro por lo tanto creo que

la responsabilidad que nos pueden pedir a unos y que pueden tener otros creo que queda sobre la mesa tres

pero me voy profundamente preocupada dudo mucho que esta proposición no de ley dentro de seis meses tenga como realidad un pts sobre la mesa para debatir los partidos políticos en comisión con la oportunidad que tendremos allí de presentar resoluciones políticas pero una vez ya se dijo que los socialistas gobernarían cuando los cerdos volaran por lo tanto me quedaré con eso para pensar

estaremos debatiendo cosas más imposibles han sucedido nada más muchas gracias

legebiltzarburu andrea señor aldaiturriaga voy a resumir lo que yo creo que usted ha venido a decir aquí desde esta

nos ha dicho yo como representante del partido nacionalista vasco

hace dieciséis años menos los últimos tres años que gobernó el partido socialista es decir

el que más responsabilidad tengo en el incumplimiento sistemático de lo que decían las dot en el año mil novecientos noventa y siete

cuando han pasado dieciséis años lo que digo es que ya no hace falta y qué pasó el primer año y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto

por qué no se hizo un plan territorial sectorial ese es el primer mensaje que nos han

el segundo mensaje que nos ha venido aquí a dar es que como la ordenación del territorio las directrices de ordenación del territorio están en estos momentos llevan ya

de revisión que empecemos de cero que nos pongamos

vaya usted a markina y dígaselo y vaya usted a deba por ejemplo y dígaselo a los vecinos de estos municipios que empecemos de cero con el tema de las canteras o se lo puede decir también al señor amantegui o al señor amenábar o al grupo instal cementi que sí que les vamos a poner el contador a cero

muchísimo ese contador no podemos empezar de cero sabiendo lo que ha pasado en todos estos años en el tema de las canteras en este país cómo vamos a empezar de cero y por otro lado lo que nos viene a decir

este tema nos viene a decir que hay que darle una solución parcial a un tema que sí o sí necesita una visión y una solución general y esa la podemos encontrar

porque en un plan territorial parcial no podemos debatir o no es el foro idóneo para debatir cuál es la necesidad general que existe y para qué tipo de infraestructuras y para responder a qué tipo de modelo de crecimiento los áridos calizos que necesitamos

para dar servicios a ese modelo de crecimiento y a esas

de un área funcional la que sea no se puede dar ese debate y ese debate seguramente se tendrá que dar también

si hacemos un plan territorial sectorial y ese es el debate que quiere que en esta cámara se dé ese es el debate que eh bildu quiere que se

porque si en el año mil novecientos noventa y siete se decía

no se decía nada de un plan territorial de infraestructuras ferroviarias y se hizo para dar cobertura a lo que entonces se llamaba la y vasca y que no sabemos cómo se va a llamar por la configuración final que va a tener

para construir lo que se ha construido y para construir lo que se pretende construir han hecho falta unas cuantas canteras o sacar piedra de unas cuantas canteras al igual que se han hecho planes territoriales

económicas y comerciales para las cuales ha hecho falta también unos cuantos millónes de piedra

el problema es que mientras esos sí han desarrollado otros planes territoriales sectoriales como el de canteras

planes que deberían de ser proteccionistas con el medio y esa es la realidad de este país y ese es el debate

quiere traer y traerá cuando respondiendo y esperemos que así sea al mandato de esta cámara tengamos ese debate en las comisiones

en primer lugar a la señora lópez de ocariz tengo que decirle que yo sinceramente creo que no me ha escuchado cuando yo he hablado yo he intentado explicarle qué es lo que ha cambiado en los últimos años para

nuestra postura porque hace dos años apoyábamos

y en la respuesta esta la respuesta que voy a dar vale también para la señora rojo y es bien sencilla

era porque el gobierno tenía incluido en su programa de gobierno en su calendario de planes

lo que se había comprometido en esta cámara eso creo que como digo

preguntado la señora lópez de ocariz nosotros no vamos a acudir señora rojo a la utilización de

anterior responsables de gobierno como lo hicieron en su momento ustedes

infundadas señora mendia en las anteriores legislaturas por usted misma

palabras descalificatorias que a nuestro juicio se vuelven en contra de la labor del propio gobierno socialista sobre esta materia pero no lo vamos hacer no vamos a acusarles de connivencia con el sector cuando simplemente lo que ocurre es que no se ha sabido gestionar esta problemática no es nuestro estilo

con el programa de gobierno que presentase el plan territorial sectorial que usted decía en la primera parte de la legislatura y no lo hicieron

su fracaso fracasaron ustedes se excedieron en sus criticas

y entendemos que ahora cuando plantean esta iniciativa vuelven a equivocarse

al señor maeztu yo a usted

usted debía saber que cuando se decide revisar la planificación nos colocamos

y esto vale también en parte para la señora ocariz que nos colocamos en el momento digamos

y ponemos a trabajar sobre esa materia cuál es la problemática hoy en día de las canteras pues eso es lo que supone la

es como si comenzase la planificación desde el momento inicial y esto señor maeztu lo propusieron ustedes hace seis meses y lo apoyamos nosotros

proponen revisar las directrices o sea volver al momento cero y en paralelo vienen aquí apoyando una iniciativa que supone

y otra cuestión usted decía hace un momento que qué ha pasado

para que no salga este asunto pues a lo mejor igual no tiene que ir muy lejos de su bancada

no la ha llevado el partido nacionalista vasco o sea que antes de lanzar

mire en primer lugar en su propia casa también decir a la señora

la señora lópez de ocariz que nosotros no es que no queramos que se regule esta materia antes al contrario

y como ya está resuelto esta problemática de las canteras a nuestro entender seguramente no a satisfacción plena de todos los grupos de esta cámara pero entendemos que con un marco razonable la problemática de las canteras en los espacios naturales

pues nos parece un factor a tener en cuenta y como digo

por la cerrazón de algunos grupos políticos entre ellos la proponente a la que todavía estoy esperando la contestación

señor aldaiturriaga efectivamente usted ha hecho una justificación en base a que ha pensado que más vale ponerse una vez rojo que cien colorado y yo lo puedo entender y me parece

señor aldaiturriaga señorías detrás de cada cantera hay nombres y apellidos

muy potentes que no son precisamente eventuales en el gobierno

este pts de canteras no les van a dejar por eso

porque este gobierno pues es flojo no tiene fuerza no tiene garra suficiente para cumplir con esta obligación dice que quieren regular de otra manera no si regulan regularán como les manden

esto es así no tiene vuelta de hoja no podemos estar veintiuno años dándole vueltas como si no viesemos nada

hagan para lo que les han elegido para gobernar no para estar eskerrik asko lópez de